me he quedado convencido de que hemos hecho un buen plan y verdaderamente en un tiempo francamente

se ha hecho en los primeros meses de esta legislatura cumpliendo un compromiso

me han hablado de la generalidad del plan sí es un objetivo en sí mismo y me han hecho muchas afirmaciones sobre aspectos muy puntuales referidos a temas concretos de enfermedades concretas que yo creo que no es el objetivo del propio plan y para eso

de hacer acciones el plan está concebido como un plan de gobierno

de este documento es un plan que asume el gobierno en su conjunto y que el seguimiento y la admisión directora del propio plan lo va a asumir

cosa que no ha pasado en ninguno de los planes anteriores con ninguno de los anteriores gobiernos y además no pasa de momento

sistemas de salud del estado es una novedad absoluta y yo creo que es una muestra clara del compromiso del gobierno con la salud de las personas de euskadi el plan aporta el concepto de transversalidad

y tenemos una organización de país con tres administraciones el gobierno vasco la administración foral y la administración

el trabajo interinstitucional no es una novedad

lo hemos visto en otros de los planes más avanzados pero no estaba desarrollado hasta ahora es una de las dificultades que va a tener pero yo creo que nadie ha discutido

es un concepto mucho más global y lo compartimos lo compartimos con la izquierda lo compartimos con ustedes lo compartimos también con la derecha no hay una discusión pero hay que ponerlo sobre la mesa

en valor no venimos a sacar pecho por poner ese concepto pero se ha puesto hay que reconocer que es así es un plan

vamos a tener evidentemente muchas dificultades

no tengan ustedes duda lo vamos a afrontar con valentía

el plan incide en el concepto de equidad y responsabilidad como no puede ser de otra manera como no puede ser de otra manera lo hemos dicho durante la primera intervención

y la mortalidad incluso que el tabaco que es el considerado la primer causa

yo creo que es de ley y así el gobierno lo asume que el plan va a intentar limar aquellos aspectos que inciden

sobre los colectivos más desfavorecidos porque evidentemente es reconocido que tiene una mayor desprotección sobre la salud

los entornos y las conductas saludables

treinta y uno años hablando de que hay que dedicar más recursos a promoción y a prevención de la salud y lo compartimos

luego la realidad es que cuando alguien gestiona sea el gobierno del color que sea no es tan fácil hacer acciones de medicina preventiva demostradas y coste efectivas esto lo sabemos nosotros tenemos una cartera que yo he relatado

de gobierno que es importante que es importante por hecho

y que exceden al propio departamento de salud pues también yo creo que es un aspecto importante lo cual no quiere decir que era uno de los riesgos que

sobre el plan de salud es sobre la salud de euskadi no es el debate no es el pleno de política general no

hay muchísimas cosas que inciden sobre la salud pero exceden de este humilde consejero otra cosa es que el plan pone también el tren en el carril para marcar políticas que otros departamentos que otras administraciones pueden hacer el objetivo del plan no es que el departamento de salud les diga a todos los demás qué es lo que tienen que hacer no no pretendemos eso y además yo estoy seguro que en eso fracasaríamos el objetivo

en ese concepto de salud es coordinarnos con el resto de departamentos con el resto de administraciones

y entre todos poner en valor la salud y desde luego seguro que se van a poder ir modificando cosas y avanzar

además el concepto de bueno o malo es un concepto siempre en comparación cuando se dice bueno o malo es comparado con qué el nuestro y he intentado relatarlo al inicio

de la política y se lo diéramos a un evaluador externo y lo comparáramos con el resto de sistemas del primer mundo que por muchas razones nuestro sistema sanitario funciona aceptablemente bien que no quiere decir que como todas las cosas tenga muchísimas áreas de mejora y afortunadamente eso es lo que nos da trabajo a los sucesivos consejeros pero funciona aceptablemente bien ahora partiendo de donde estamos

y del envejecimiento al que nos vamos a enfrentar pues para mantener y mejorar esos ratios de salud es algo más

es algo más que poner ginecólogos en cada pueblo es algo más que atender bien a lo que nos llega al sistema sanitario es algo más que eso y ahí yo creo que

es visualizarlo y ponerlo sobre la mesa

pone en valor la atención primaria y no nos duelen prendas en decirlo esto también pasa un poco como la promoción y la prevención es más fácil poner en valor la atención primaria que luego potenciarla cada día a día es más difícil pero bueno ahí está

de incrementar el porcentaje de gasto en atención primaria

si el ginecólogo de llodio que hace atención a la mujer en primera instancia

dedicado a la atención primaria sube si eso se contabiliza en el hospital o en la osi barrualde

no vamos a hacernos trampas cuando nos comparamos con el resto de comunidades o cuando nos comparamos internacionalmente a la hora de contabilizar cuáles son los porcentajes de atención primaria hay que poner

si el veinte por ciento del gasto sanitario del departamento de salud que es la farmacia por receta farmacia ambulatoria

comunitaria se contabiliza como atención primaria pues entonces nos disparamos entonces no solo vale la frase bonita de decir hay que incrementar el porcentaje

que nosotros tenemos no ha salido o ha salido parceladamente una de las principales líneas políticas de esta legislatura y creo que en algunos aspectos también

la integración de la asistencia sanitaria yo lo digo muchas veces creo que tenemos un buen sistema sanitario creo que tenemos hospitales que con sus problemas cómo no

creo que tenemos atención primaria que funciona aceptablemente bien pero también creo que después de treinta y uno años hasta aquí hemos llegado y el convivir frente con frente o espalda con espalda como ustedes quieran llamarlo ser muy difícil mejorar más yo estoy convencido que no va a ser este consejero

van a hacer falta más años pero si espero ser el consejero que termine con la integración del conjunto de la población

el coche en carril nosotros socialmente

cómo funciona el sistema sanitario creo que diría que aceptablemente bien y tenemos un sistema sanitario con una creo que importante accesibilidad y con una aportación individual a la hora de recibir las prestaciones sanitarias baja

y además es un sistema centralizado en su gestión desde gobierno y financiado íntegramente por impuestos hace muchos años que el sistema sanitario no se financia a través de la seguridad social tenemos un sistema social yo creo que bueno

con posterioridad ha elegido un camino distinto no va a una integración de recursos que va a gestionar el gobierno sino que está gestionado a través de las diputaciones y los ayuntamientos

la mayor parte de los proveedores son privados y además tiene una aportación en el coste por parte de las personas mucho mayor en el sistema sanitario y además creo que también la población coincide

tiene unos buenos resultados por lo tanto tenemos dos buenos sistemas con características sustancialmente distintas el objetivo de este departamento no es cambiar

con la esperanza de vida que tenemos un logro social no solo del sistema sanitario y con el envejecimiento que nos espera la mejor coordinación entre los servicios sanitarios y los servicios sociales es un objetivo ineludible y es un objetivo que se ha formulado pero no se ha trabajado previamente

y ahí también yo creo que el plan tiene la bondad la virtualidad y el acierto de

sobre la mesa y además es un trabajo forzosamente interinstitucional nosotros nos creemos el plan me han dicho aquí hemos pensado que era un documento más en el buzón

me ha faltado oír el sistema sanitario funciona bien tiene treinta y uno años ha sido solo gestionado por dos partidos de esta cámara por lo tanto algún mérito tendremos

no ha crecido de la noche a la mañana igual es que cuando otros estaban en otra cosa nosotros ya lo estábamos gestionando y por eso hemos llegado aquí entonces eso también hay que reconocerlo

por lo tanto no tengan ustedes duda de que vamos a continuar avanzando por esa línea y de que ese documento en el buzón lo hemos escrito porque nos lo creemos

como cualquier plan estratégico pues tendrá una serie de cosas que se han cumplido y otras no seguro pero en cualquier caso ya verá usted como se cumple y además nos vamos a empeñar en ello han salido temas de seguimiento yo creo que el seguimiento lo hemos planteado claramente

desigual en los tres planes de salud que hemos tenido previamente nosotros tenemos el compromiso de hacer el seguimiento a través de los órganos definidos

y tenemos la voluntad de traer los informes anuales a esta cámara sí tenemos la voluntad de que se hagan y traerlos y estoy seguro que ya verán como alguno en vez de doce meses

pero bueno la voluntad es esa y se ha hecho con eso han salido

puntos el tema presupuestario el tema presupuestario

muy importante nosotros somos ha salido lo he dicho en la exposición algo por encima del nueve por ciento del producto interior bruto en gasto

y de otras instituciones y de los propios ciudadanos asistencia dental farmacia etcétera

de que siempre el sistema sanitario va a sentir y va a tener necesidad de más dinero esto es una constante desde que yo lo conozco y también estoy convencido

siempre ha sido suficiente incluido esta legislatura que está siendo muy difícil está siendo muy difícil pero

seamos más torpes o menos que el anterior o que el anterior del anterior

que los anteriores sino porque no somos capaces de cambiar las circunstancias económicas en la que estamos viviendo intentamos gestionarlas de la mejor manera posible y este plan está inmerso en estas circunstancias yo cuando oigo de forma permanente la palabra recortes pues yo como mi cara es bastante espejo de lo que pienso

yo me gustaría que alguien suba a esta tribuna y algún día me enumere los recortes

de los que le caben en los dedos de una mano no veo yo tanto recortes y luego volvemos al mismo principio de antes cuando alguien dice más y menos quiere decir que nos está comparando con algo pues que cuando se hable de eso que nos diga con quién

para aprender y luego hombre en este país las tres administraciones estamos gobernados

es que hay algún ayuntamiento que no tenga más necesidades de las que puede abordar con el presupuesto que tiene es que caen melones del cielo en alguno de los ayuntamientos pues le pasará lo mismo que a mí cuál es el mérito pues intentar hacer lo mejor posible con lo que tenemos

ahí está no lo voy a valorar yo ahí está que lo valoren los ciudadanos yo creo que en ese aspecto

no puede ser de otra forma pero créanme bastante bastante retórica

entrando en ya en concreto en algunas de las cuestiones más

que me han apuntado me ha apuntado el señor maneiro y se lo agradezco aspectos muy positivos y verdaderamente se lo agradezco me ha apuntado un aspecto que me va a dar pie a una reflexión interesante

yo creo que el objetivo de nuestro plan de salud no puede ser la vida eterna o sea tenemos una esperanza de vida de las

llegar al final en las mejores condiciones posibles y que la esperanza de vida libre de discapacidad

se aproximen el objetivo no es tanto continuar alargando la esperanza de vida sino

y residiendo con la mayor autonomía posible en el domicilio habitual que tenemos cada uno que es un objetivo no solo del sistema sanitario

me ha calificado de preocupante el que no haya un objetivo de reducción de lista de espera yo la lista de espera me preocupa porque tiene una relación directa con cada ciudadano y con que cada ciudadano

pues siempre es preocupante pero no yo creo que el plan de salud no está ahí el problema del plan de salud

y ya lo planteé en las líneas generales de la legislatura me ha planteado que el plan es poco ambicioso en investigación e innovación

me lo esperaba e incluso le agradezco que no me haya hecho la referencia biocruces pero creo

lo mismo la investigación y la innovación no van a resolver nuestros problemas de salud en los próximos siete años que son los que tiene el plan de salud de vigencia sin que quiera decir que no le vamos a dedicar tiempo recursos y gestión a la innovación e investigación como ya lo estamos haciendo

reflexión sobre que el gobierno no cree en la integración y no pone en valor la cronicidad creo que es injusto creo que si hay algún gobierno que ha hecho más por la integración

cuántos ciudadanos antes del diecisiete de diciembre tenían una atención sanitaria integrada en euskadi en osakidetza y cuántos tienen a día de hoy es una cuenta

creo que ahí estamos apostando con nitidez no creo que no estemos apostando por la cronicidad no creo que sea este consejero el que no ha puesto en valor la estrategia de cronicidad aplicada antes siempre he dicho que yo creo que la cronicidad es consecuencia de la vejez

y qué es vejez cronicidad y dependencia pero creo que estamos intentando mantener

y consideramos muy positivos de la cronicidad yo he conocido a osakidetza durante mucho tiempo haciendo

y ha habido un valor que ha sido ponerlo en forma de estrategia y darle valor le he oído a la señora roncal y tengo que decirlo yo creo

de los cuales nosotros hemos estado veinticuatro en el gobierno todas las legislaturas para mi todas han sido muy importantes

del sistema sanitario público universal y de calidad fuera exclusivamente suya porque tiene mucha aceptación social pero mire en euskadi esa bandera es del conjunto ni siquiera quien en otras comunidades lo discute aquí lo discute

me alegro de que sea un logro social espero que sigamos compartiéndola

ninguna novedad llevamos en eso veinticuatro años el sistema sanitaria para mí tiene dos hitos legales importantes la ley de creación de osakidetza que fue de mayo del año mil novecientos ochenta y tres fue una ley importantísima moderna hoy treinta y uno años después integró los recursos sanitarios de algo que no teníamos transferido que era el insalud

y buscó una concepción integral del sistema algo hecho en el año ochenta y tres la otra ley que para mí tiene un valor importante fue la ley de ordenación sanitaria que es del año noventa y siete y era un gobierno de coalición pero había un consejero nacionalista en el departamento entonces sanidad es la ley que separó la provisión de la financiación y es la ley que nos convirtió en el ente público que somos hoy y que nos ha dado a los sucesivos gobiernos un margen de flexibilidad para gestionar y yo ahora que me mueve el entorno lakua completamente distinto

el partido popular se ha centrado en un discurso

me suele hacer también de forma habitual y que me viene bien nosotros no desmerecemos los sistemas de salud de ninguna comunidad es más creemos que han mejorado en distinto tiempo que nosotros

y además nos congratulamos de ello nosotros hemos sido referencia durante mucho tiempo y creo que lo seguimos siendo y tampoco creo que sea mérito mío pero creo que es así

es normal que a medida que se troceó el insalud y se fue transfiriendo

a cada una de las comunidades mejoraran es normal es la demostración fehaciente de que lo que se hizo con el país vasco

con el estatuto era una

ni nos parece de menos para nuestro sistema el que los demás mejoren ni nos parece que hayamos perdido la referencialidad estoy seguro que no me ha hecho lo mismo me ha puntualizado sobre todo en las cintas sobre

lo genérico del plan y sobre la accesibilidad creo que a lo de genérico he contestado

aunque el plan pone el foco en la existencia de desigualdades sociales en el acceso a la salud que además de ser verdad cada vez que se hace un estudio hay pocos al respecto pero cada vez que se hace un estudio

y también cada vez que se hace un estudio desde la dirección de salud pública

que aunque tenemos un sistema bastante equitativo y bastante homogéneo también mantenemos problemas

nosotros tenemos varias ventajas somos un país pequeño tenemos

en cada barrio o en cada pueblo hay menos de una hora desde cualquier punto del país a un gran hospital universitario terciario tenemos una red excelente de centros de salud mental y además con una apuesta nítida desde hace mucho tiempo

extrahospitalaria por lo tanto yo creo que si alguien nos valorara de fuera y no fuéramos nosotros en la discusión política uno de los grandes éxitos de osakidetza ha sido la accesibilidad que

seguir profundizando en ella y que ahora con la disculpa de la crisis no somos nosotros los que estamos intentado recentralizar el sistema sanitario

ni el de otros que no pasa lo mismo en todos los sitios pero no creo que nuestro pecado ni el problema que tenemos aquí sea el de accesibilidad lo cual no quiere decir que hay que seguir

le voy a dar la razón a la señora garrido en el tema de la participación ciudadana y la orientación de los servicios por parte de los ciudadanos la participación ciudadana está

que el sistema sanitario tenía que funcionar y realmente ahí creo que no hemos tenido suficiente éxito y creo que la mayor parte de las medidas

tengan más voz en la orientación de los servicios sanitarios que reciben con independencia de la voz desde sus representantes políticos es baja

que es un aspecto a trabajar lo planteamos también cuando hicimos las líneas generales y también debo reconocer que no es un aspecto fácil de trabajar pero lo tenemos en la cartera ha tocado usted también el tema de los profesionales sanitarios yo lo digo siempre porque además

me siento unos de ellos nosotros somos personas que atendemos personas

mantenga un elevado nivel de ilusión compromiso y aceptación de los objetivos del sistema sanitario en su conjunto

y que funciona bien la mayor parte de la gente lo primero que valora

es el trato y sin embargo pues corren tiempo difíciles corren tiempos difíciles incomunicación con sus representantes legales la parte sindical pese a que la trabajamos supongo que cometeremos errores no es fácil y creo que el momento tampoco

no creo que la desmotivación sea la principal característica de nuestros profesionales me he apuntalado varias cosas

cáncer enfermedad cardiovascular y salud mental con cáncer es otro de

en todos los programas de salud y realmente no hemos tenido éxito en conseguir una atención el cáncer

pero no hemos tenido un gran éxito en la integración del paciente oncológico y la mejor coordinación entre la atención primaria y la atención especializada

el abordaje multidisciplinar del cáncer no ha sido una

virtudes y en ello estamos yo creo que ahora mismo en los

cuatro grandes hospitales terciarios con una cartera de servicios

los cuatro tienen el proyecto de trabajar más el abordaje multidisciplinar y desde luego con el oncológico en gipuzkoa también así lo estamos haciendo

son la primera causa de mortalidad en la mujer y la segunda en el hombre y sin embargo

y probablemente no se puede hacer de otra forma en cualquier país del primer mundo que usted lo mire es así yo creo que

y el resto del abordaje de la patología cardiovascular para las diferentes técnicas

a ningún otro sistema sanitario del mundo con salud mental la salud mental nunca hay que perderla de vista es un área muy importante yo creo que desde hace un montón de años el enfoque extrahospitalario que tenemos es el adecuado y además el enfoque

de la mano de los servicios sociales también es muy importante pero yo creo que tiene un capítulo en el plan de salud como el que merece y desde luego

creo que ya le he contestado de lo que me ha planteado

compartir con usted completamente la bandera del público de calidad y los principios de la ley de ordenación sanitaria a veces parece que el que lo compartamos

que de otra cosa pero es así usted lo sabe usted lo sabe que los compartimos hemos utilizado documentos que se realizaron en la anterior legislatura y en la anterior de la anterior cómo no podría ser de ninguna otra manera porque no son documentos de ningún gobierno son documentos

de este país entonces no se nos debería perdonar que nos hubiéramos dejado alguno yo creo que se nos debe valorar su propia utilización no se nos ha olvidado la vivienda la vivienda está en la ley de servicios sociales está en la ley de garantía de ingresos y además hay el compromiso

por lo tanto yo creo que no es el ámbito del plan de salud el del hacer el tótem de la vivienda sin ningún género de dudas la vivienda contribuye a la salud de las personas

está suficientemente contemplado acabando

a mi modo de ver excesivamente fuerte para luego acabar reconociendo que el plan de salud es el que le hubiera gustado hacer

pero es así pero nos tocaba hacerlo a nosotros

tantas diferencias ha hecho usted una reflexión que sí que la he apuntado porque el mayor tesoro no es la salud no el mayor tesoro es la vida la salud viene después

carencias me ha hablado de generalidad creo que ya lo he contestado

yo creo que el plan de salud no puede salirse del entorno que le va a tocar vivir pero va a estar encajado

de que el gobierno le va a dedicar los medios económicos que tiene y puede y no le va a dedicar ni los que no tiene ni los que no puede por otro lado de los dos presupuestos que este gobierno ha presentado

por lo tanto tampoco nos han pedido más simplemente nos han dicho que no les gustaban

no son solo los del gobierno sí van a ser también los de otras instituciones me ha planteado que necesitamos más personas en el departamento de salud pública yo creo que eso es fruto de su desconocimiento si hay algoque tenemos en el departamento de salud

es personas ahí no tenemos ninguna carencia cuando quiera le explico la dotación que tenemos

algún ginecólogo en algún sitio es posible que podamos dedicar más

que no en el ámbito del departamento ahí tenga usted seguro que no tenemos una dificultad de recursos económicos

con que los recortes en los recursos humanos son la incertidumbre

este plan de salud la bajada del presupuesto sanitario en el departamento de salud no ha empezado

con respecto al presupuestos del dos mil doce no lo critico

obedece a las circunstancias que tiene pero no ha empezado ahí segundo nosotros este año con los datos en la mano y se lo explicaré cuando quiera

se está trabajando más horas no hubo días moscosos ni canosos y el porcentaje que hemos contratado hemos tenido todo el año más gente trabajando que los años anteriores

el recorte es cuánta gente trabaja para el sistema me ha apuntado lo del calendario

y a mí también vamos a poner todo el énfasis en eso y creo que lo tendrá poco más agradecer al grupo

el apoyo el relato de las medidas que hemos ido tomando en el tiempo que llevamos gobernando

y es en lo que vamos a seguir lehen azaldu dudan moduan euskadin bizi garen

me alegra saber que usted saldrá feliz del pleno creo que todos lo agradeceremos y especialmente su propia salud creo que

ni la crítica destructiva ni la autocomplacencia creo que el plan está ahí contiene elementos muy positivos

determinadas críticas e incluso también hemos planteado propuestas

observaremos en las propuestas de resolución distintos grupos en ese sentido creo que los distintos grupos también han presentado propuestas interesantes que creo que el gobierno vasco

nosotros valoramos el esfuerzo realizado por usted por su departamento y por el gobierno compartimos los objetivos del plan y los principios que se defienden especialmente la lucha contra las desigualdades reconocemos también que disponemos en euskadi de unos buenos servicios sanitarios y de una buena sanidad creo que esto lo reconocemos todos aunque por otro lado también lógicamente estos

sanidad pues también es algo que puede mejorarse en fin

pero también ahí están los recortes aplicados por este gobierno y creo que hay que dar la vuelta a determinadas decisiones que se han tomado en los últimos ejercicios y a la vez también mejorar la eficacia y la eficiencia

creo que ni la crisis económica ni el margen que efectivamente existe para mejorar la eficacia y la eficiencia del sistema pueden ser excusas para aplicar recortes o reducciones presupuestarias y ustedes

también aquí esos recortes en el uso de sus competencias usted lo conoce perfectamente sabe que esto es así el mérito por lo tanto sería destinar los recursos a lo importante y creo que en euskadi no se hace todavía esto hay mucho margen de mejora no quiero poner ningún ejemplo en concreto que le afectaría directamente a usted pero es evidente que hay

destinar los recursos públicos a lo realmente importante y dejar determinadas cuestiones al margen además de impulsar determinadas reformas para ya digo lograr este objetivo por lo tanto no aceptamos

determinados recortes en sanidad aplicados ya digo no solamente por el gobierno de españa sino también por parte de este gobierno no los aceptamos en ningún caso no hay excusa para

importantes hemos señalado las listas de espera da la sensación de que usted ha planteado que este asunto no es algo

hemos puesto encima de la mesa también el fortalecimiento de la investigación y de la innovación daba la sensación también que usted planteaba que no es un asunto tan importante nosotros pensamos que contribuiría en avanzar en ese objetivo que compartimos de esperanza de vida libre de discapacidad

hay mucho donde avanzar por eso hemos querido señalar este reto el fortalecimiento de la investigación y de la innovación y desde luego hemos hablado mejorar seguir mejorando si se quiere la integración que debe presidir la atención socio sanitaria algunas cosas hemos dicho en relación a esta cuestión y evidentemente continuar la estrategia de crónicos puesta en marcha la pasada legislatura yo le planteaba también y se lo he planteado

en cáncer en euskadi siguiendo las recomendaciones de la estrategia en cáncer del sistema nacional de salud y de la propia unión europea usted no me ha respondido a esta

observaré su rostro para ver qué es lo que piensa en relación a esta cuestión porque decía antes que su rostro

observaré su rostro a ver qué es lo que le parece esta propuesta veo que sonríe quizás lo está pensando en todo caso luego en el turno de réplica me lo explica para ya digo saber también qué es lo que piensa el gobierno

a mantener un diálogo pero sin contraponer opiniones que no nos dediquemos únicamente a votar luego las propuestas de resolución esa es una propuesta que nosotros hemos planteado y plantearemos luego y también he hablado de atender a otra serie de cuestiones relevantes y a determinadas enfermedades ni mu ha dicho tampoco en relación a esta cuestión ya digo enfermedades raras fibromialgias síndrome de fatiga crónica política de transplantes enfermedades degenerativas

lo relacionado con el consumo de drogas en relación a esta cuestión tampoco ha dicho nada y en particular nos ha causado asombro supongo que habrá sido un desliz escucharle hablar de enfermedades concretas no es objeto del plan

debería serlo más allá de articular un plan general sobre la cuestión hablar de determinadas enfermedades concretas creo que sí debería ser uno de los objetos

alguna cuestión y no nos ha contestado tampoco nos ha contestado a nuestra propuesta de introducir una nueva área prioritaria que denominaríamos salud y medioambiente

pero pensamos que puede ser una propuesta novedosa y ciertamente avanzada que en algunos otros lugares del mundo se está poniendo en marcha introducir una nueva área prioritaria que denominaríamos salud y medioambiente con el objetivo de identificar los riesgos medioambientales para la salud

para minimizarlos creo que es una cuestión interesante lógicamente en el ámbito de nuestras competencias creo que ahí se podrían hacer cuestiones y propuestas interesantes y también hemos hablado de la necesidad de introducir el control parlamentario el seguimiento parlamentario de este plan del cumplimiento de sus objetivos

usted no nos ha respondido y nos gustaría que en el turno de réplica pudiéramos conocer su opinión en relación a estas cosas que nosotros hemos planteado también tenemos que decir que el resto de grupos ha planteado una serie de propuestas interesantes y creo que han realizado también reflexiones dignas

apoyaríamos por lo tanto esas propuestas de resolución que recogieran esas propuestas concretas de los diferentes grupos y esperamos que el gobierno y en particular el grupo que apoya al gobierno

para todos en definitiva nuestro objetivo es tener una sanidad pública señor consejero una sanidad de calidad una sanidad equitativa no solamente observando lo que ocurre en euskadi sino lo que ocurre en el conjunto de españa y lo que ocurre en el conjunto de europa una sanidad realmente equitativa y una sanidad universal

de los recortes de quienes con la excusa de la crisis están dispuestos a privatizarlo todo y a arrumbar con el estado del bienestar

tenemos ese riesgo la predisposición de determinados gobiernos

con recortes sociales recortes sanitarios o privatizaciones es un riesgo que está ahí y nosotros tenemos que impulsar todas las medidas que sean necesarias para

a esa amenaza en fin señor consejero esto es lo que nosotros proponemos nada más y gracias

eskerrik asko presidente andrea egun on berriro bueno voy a hacer referencia a algunas cuestiones que ha comentado el consejero y también hacer hincapié en algunas ideas que creo que son importantes y en las que

que no pueda reparar obviamente en todos los aspectos que hemos dicho pero que igual pues merecen también

nuevamente en cuanto a las aportaciones específicas usted nos decía que si bien pueden ser temas relevantes que no considera que son objeto

a planes estrategias o propuestas concretas que hemos plasmado los diferentes grupos o que vamos a plasmar en nuestras propuestas de resolución

en relación a varias cuestiones y sobre todo en cuestiones que han sido ya debatidas en este parlamento que el gobierno vasco tiene deberes y que a día de hoy

y todavía no han sido elaborados por el gobierno vasco y en consecuencia remitidos al parlamento en ese sentido lo hemos considerado oportuno incluir del mismo modo

departamento el gobierno en este plan pues incluía algún plan específico por ejemplo el referido a la actividad física o el plan de prevención también relacionado con la alimentación saludable

que este plan de gobierno es un compromiso que adquiere en primera persona el lehendakari me parece una cuestión importante

mayor inconveniente en definitiva y en consecuencia con esa afirmación recoger una de las propuestas concretas que plantea el partido popular que vaya relacionada con la evaluación periódica de este plan anualmente que se realice una revisión anual del plan y se remita al parlamento y la conozcamos en el parlamento y la debatamos en su caso y la valoremos

de siete años también en periodo anterior del plan anterior dos mil dos dos mil diez era un periodo amplio de vigencia
y como decía isiltasuna mesedez isiltasuna

el señor inclán vino dos veces al parlamento y luego el señor bengoa siendo

anterior compareció para hacer otra evaluación pero nosotros no queremos que esa historia se repita en relación

que anualmente se puedan realizar ese seguimiento de esa evaluación tampoco creemos que es obstáculo y por lo tanto que será aceptada por el gobierno dado que es un compromiso que

económicamente de alguna forma las acciones que se contemplan en este plan para cumplir los objetivos fijados hacía usted referencia al tema de la accesibilidad

que efectivamente es una idea importante y vinculada a la equidad nosotros la entendemos así porque al final

no tendría sentido si el sistema sanitario no es accesible y aquí podemos traer a colación el ejemplo de las listas de espera es decir si hablamos de equidad pero luego el sistema no es accesible

con demoras específicas muy largas pues obviamente el sistema no es accesible y por lo tanto no se puede desarrollar en su

el acceso a la asistencia sanitaria por parte de colectivos vulnerables o que tienen una especial vulnerabilidad o colectivos

que tienen circunstancias especiales y que viven por ejemplo en zonas también muy concretas el señor consejero hacía referencia

lo ponía en valor la cuestión concreta de la comunidad autónomas del país vasco euskadi no es una comunidad muy grande efectivamente pero a la vez también hay que decir

a determinados servicios sanitarios se complica por eso nosotros también hemos

en el ámbito rural al ámbito sanitario en cuanto a la atención primaria yo le he dado una importancia y de hecho he señalado que es una de las cuestiones

y por eso muchas de las políticas en materia de prevención concretas que hemos recogido que vamos a plasmar en propuestas de resolución concretas

de la atención primaria por ser precisamente la puerta de entrada o el nivel asistencial con el que más contacto o el primer nivel asistencial con el que tienen contacto

ciudadanos cuando hablaba usted también de integración de la asistencia sanitaria nosotros hemos hablado de atención integral en un aspecto concreto que es en el tema de la asistencia de carácter integral una atención además multidisciplinar a los enfermos de cáncer lo hemos recogido así expresamente también en otra propuesta

en cuanto a la participación para nosotros es un eje fundamental y por ello

propuestas relacionadas a incidir en el ámbito de la participación a incidir en el mayor protagonismo que tiene que tener el ciudadano en las cuestiones que afectan a su salud con fomentar el autocuidado la responsabilidad la educación en salud que en definitiva también inciden claramente en la

de riesgo que pueden ser desencadenantes de ciertas patologías

sin duda compartimos la idea como no podía ser de otra forma del valor que tienen los profesionales

sanidad por eso creemos que también a los profesionales hay que dejarles

la despolitización de los gestores que tienen que ver

los distintos niveles del sistema sanitario en relación al cáncer ya me he referido en relación a las enfermedades cardiovasculares que yo creo que este es asunto que además ha sido debatido a través de numerosas iniciativas y algunas de ellas a propuesta

ámbito importante y sobre todo la incidencia que tienen las enfermedades cardiovasculares la importancia de la prevención ustedes en este apartado se remiten al apartado específico de la prevención en general pero nosotros sí que consideramos conveniente que

enfermedades cardiovasculares hagamos una referencia a la prevención cardiovascular pero de carácter multidisciplinar es decir que tengamos en cuenta todos los factores que pueden incidir al final en que se pueda dar una patología en este ámbito

una enfermedad cardiovascular o algún problema cardiovascular

físico el tema del tabaco el tema del alcohol también hablamos de la rehabilitación es que consideramos muy importante la rehabilitación de estos enfermos y sobre todo una vez que se produce el alta hospitalaria consideramos que tiene que haber una rehabilitación específica al final

sin más hospitalaria con una serie de consejos

para ver si se da cumplimiento a esos consejos

en el alta de estos enfermos y por eso hablamos de la

tres y luego finalmente no me ha prestado mucha atención a cuestiones concretas a las que me hacía referencia como un plan específico para el control de la osteoporosis

hacía referencia también a protocolos en el ámbito de la fibromialgia y síndrome de fatiga crónica también hacía referencia a las

raras a su abordaje de forma integral y finalmente en el tema de la cronicidad sí tenemos algunas propuestas concretas a las que

sí se me había olvidado mencionar una cuestión que traigo a colación en estos momentos que es el tema también de la estratificación del riesgo de la población es una cuestión que se inició en la legislatura pasada que nosotros valoramos de forma muy positiva y nos parece conveniente que se siga

en esa línea tener estratificada la población por riesgos y también en aras

del sistema y una mejor calidad asistencial y en el asunto concreto de la investigación pues le damos mucha importancia porque

dinámico se ve claramente influenciado por procesos de cambio tanto en la tecnología que se puede utilizar como en sus procesos operativos y en los servicios que desarrolla y oferta propiamente dicha y voy acabando señora presidenta consideramos que hay márgenes de mejora

aquí se han hecho ajustes y ajustes importantes en los presupuestos en políticas sanitarias concretas y consideramos que hay margen porque nosotros una vez

concretas mejoras en el ámbito sanitario y esas cantidades provienen de otros ámbitos que sin duda desde la perspectiva del partido popular se pueden priorizar se pueden priorizar y hay otras muchas partidas que directamente se pueden eliminar o reducir

para derivarlas al ámbito de la salud eta besterik gabe eskerrik asko y desde luego pues esperamos que miren con la debida atención las propuestas del partido popular y el objeto de las mismas ha sido aportar

y que este plan de salud nos parece muy adecuado y que lo vamos a apoyar no se enfade tanto por lo menos lo parece

coincidan y tengan esta valoración y este aprecio socialdemócrata

eso nos satisface profundamente también tengo que decirle

en trabajar en determinado aspecto ni medimos el éxito de la sanidad actual por los años gobernados por unos u otros partidos sino por la voluntado política de hacer cosas y sobre todo de utilizar el autogobierno

es precisamente apreciado por esta sociedad gracias a los resultados que ha obtenido por lo menos en términos de sanidad y de salud de la población creo que la sanidad ha sido uno de los elementos claves para la apreciación del autogobierno tome nota que haciendo uso del autogobierno

le vuelvo a reconocer la ley de osakidetza del ochenta y tres me parece estupenda pero claro era voluntarista

algo que no se tenía pero tendrá que reconocerme que en el año ochenta y siete las transferencias realizadas en aquel momento con la integración real de diferentes servicios

en fin un montón de programas novedosos nuevos y punteros no solo en euskadi como usted sabe muy bien en toda españa

de los médicos de atención primaria en una atención primaria a la sociedad y colectiva con formación específica en inglaterra que estaba mucho más desarrollada

por un consejero socialista y cuando me he referido al resultado de la sanidad actual no he hablado de la aportación socialista le he mencionado consenso político y social

y el resto de los grupos parlamentarios lo hicieron desde el parlamento a través de aportaciones críticas y aportaciones constructivas

para la concepción de este plan de salud nunca

en esta comunidad como aportación exclusiva de ningún grupo en particular porque creo como digo que han sido fruto del consenso del esfuerzo de la voluntad política tanto de los que gobernaban como de los que desde el parlamento impulsaban apoyaban y dotaban económicamente mediante las aprobaciones de los presupuestos

valoración anual de los objetivos alcanzados y ya le digo que vaya preparándose para el próximo octubre

querremos tener un debate con usted previo a la

evidentemente y valoradas económicamente acciones recogidas en este plan y que nos gustaría tener con usted ese acercamiento antes de lo que es la valoración exclusiva en términos presupuestarios y tengo que terminar diciéndole que

nosotros le damos mucha importancia a la investigación no solo como mejora de los procedimientos actuales de sanidad también como mejora del conocimiento porque eso facilita la mejora de las prácticas sanitarias que se hacen

o del personas sanitario también por la incorporación de nuevas tecnologías

mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y por otro lado y sobre todo a la larga mejoran la eficiencia sanitaria

un esfuerzo de inversión a la larga suponen eficiencia de los costes todo lo demás estoy segura de que y desde aquí me dirijo al resto de los grupos parlamentarios porque hemos tenido una coincidencia generalizada en la apreciación del plan y creo por lo tanto nuestras propuestas de resolución

debatidas entre todos y estoy segura que mayoritariamente acordadas por eso emplazo desde aquí a todos los grupos a que tengamos una reunión un poco general para poder acordar las prácticas y si logramos un acuerdo mayoritario

este gobierno está cumpliendo el compromiso de garantizar el derecho a la protección de la salud

de mantener nuestro sistema público de salud a pesar del contexto de crisis

del gobierno de españa esas que laminan nuestro autogobierno y perjudican nuestras competencias en materia sanitaria señora roncal ese autogobierno que ustedes como izquierda nacionalista española defiende con mayor o menor vehemencia en función de quién esté en la moncloa baina gu gurera

aitzindaria dugu urkullu lehendakariaren jaurlaritza tal y como he defendido en mi anterior intervención

fue cambiar la denominación del departamento que hasta hace bien poco la conocíamos como de sanidad y sustituirlo por el de salud

concepto de salud es mucho más amplio que el concepto de sanidad y nosotros y junto con el resto de los grupos compartimos ese planteamiento que hemos defendido

es el punto de partida el de tomar la salud como un derecho humano pero al mismo tiempo una responsabilidad individual y colectiva eta helburu horiek guztiak benetako

emandako hitza beteko duelakoan es por eso

generalidades etcétera me gustaría señalar que el plan también contempla acciones concretas orientadas a lograr resultados en salud

es un plan estratégico el plan de salud establece objetivos y estrategias para mejorar la salud pero además existen muchas medidas y acciones concretas que ya están en marcha

plan de salud ha sido una prioridad de este gobierno desde que tomo posesión ha transcurrido menos de un año entre la toma de posesión

y su aprobación el plan como os he dicho anteriormente

se hizo un trabajo durante el año dos mil doce en el cual participaron numerosos agentes y profesionales a los cuales

por lo tanto el periodo de vigencia del plan se extiende hasta el año dos mil veinte

de seis años y aun así los indicadores de resultados en salud están perfectamente medidos han sido diseñados por profesionales del ámbito de la salud como exponente del compromiso real adquirido

y contrastar los logros y objetivos fijados en un principio en consecuencia habrá que introducir modificaciones adaptaciones

que se vayan obteniendo que seguramente servirán para corregir para matizar para encauzar de alguna manera las previsiones que se recogen en este plan

y que será remitido a esta cámara en ese sentido este es un plan en línea con las políticas más avanzadas en la unión europea en el ámbito de la salud este plan

para impulsar la acción intersectorial como estrategia transversal del gobierno y además me gustaría también insistir

de hacer un uso racional de los recursos del sistema sanitario público

para ello prevé una serie de iniciativas una serie de líneas de actuación me gustaría destacar